se da una solución equilibrada y razonable a la situación creada por la resolución del tribunal constitucional del once de diciembre pasado

e impulsa la promoción de la economía vasca fomentando o promoviendo la demanda privada una solución a qué resumiendo un cambio en el calendario del abono de las pagas extras en el sector público nada más o dicho de otra forma

para disimular la asunción del ejecutivo de dar

del dos mil doce o lo que es lo mismo la reducción del salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público

sin convocar la mesa de función pública y sin dialogar con la representación sindical tal como lo fueron denunciando los diferentes sindicatos en enero este grupo parlamentario eh bildu supo que el ejecutivo de lakua estaba barajando la posibilidad de solicitar lo siguiente

de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública de la comunidad autónoma vasca

se finalizaron antes de que se suspendiera el abono de la misma es decir antes del once de diciembre la mayoría de estos se han realizado además entre personal empleado público dependientes de educación y sanidad donde la contratación eventual es una práctica muy extendida

se plantee exigir a estas personas la devolución de una parte de su salario

siempre pero más aún en estos tiempos que corren para que además les pidan devolver de su finiquito de su salario en definitiva inmediatamente después de conocer estas intenciones exactamente el quince de enero este grupo presentó una proposición no de ley para su debate urgente

sin posibilidad de dar marcha atrás y aquí estamos

proponemos mediante esta proposición lo que solicitamos al parlamento vasco es por un lado a que inste al gobierno vasco a adquirir el compromiso

correspondiente a la parte proporcional de la paga de navidad del dos mil doce y por otro lado a que adopte el compromiso de recuperar en el año

a las trabajadoras y trabajadores públicos en el año dos mil doce

ningún recorte en su salario total ninguna vulneración de sus derechos y en este punto es preciso recordar que en los últimos años en los últimos tres años ya han visto reducida su capacidad adquisitiva en un veinte por ciento y por último también solicitamos que al objeto de tratar esta y otras cuestiones que afectan a los derechos laborales del personal empleado público

medidas que vulneran dichos derechos y además porque las condiciones laborales de los trabajadores de las trabajadoras

quiero admitir que somos conscientes de que este gobierno ya ha marcado en su agenda este punto pero queremos insistir en la importancia

y que no sea una mera declaración de intenciones porque este debe ser el cauce y no otro

que ataña directamente a las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público vasco como todas las aquí presentes

ha remitido ya una carta a sesenta trabajadoras eventuales para reclamarles la devolución de la parte de la paga extraordinaria de navidad

a las arcas públicas y el gobierno vasco va a esperar al pronunciamiento del tribunal constitucional

seguirá este gobierno la misma dirección que ha tomado el pnv en bizkaia

que siga respondiendo favorablemente a las imposiciones y recortes que llegan desde madrid y más aún que se apliquen las medidas de rajoy

de los derechos laborales que a pesar de ser reguladas vía

por la actual situación de crisis son medidas que no suponen más que la supresión de derechos laborales logrados tras y años de reivindicaciones sindicales por parte de los trabajadores y trabajadoras derechos suprimidos y con muy pocos visos además de ser restituidos

el rumbo de la aceptación esan genuen abenduan

guztioi hemos firmado una enmienda transaccional los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos en la que se recogen todo lo que desde nuestro grupo consideramos que es esencial

todos los grupos de esta cámara estarán de acuerdo es en la defensa de las competencias de esta comunidad autónoma porque el real decreto ley del gobierno de españa el veinte barra dos mil doce como saben ustedes invoca

el ciento cuarenta y nueve y el ciento cincuenta y seis que hablan de la planificación económica general del estado y del régimen estatutario de los funcionarios y en un rápido vistazo hay que decir que la supresión de la paga extra en los términos que el real decreto impone sobrepasa la competencia estatal porque no respeta ni siquiera la jurisprudencia propia del tribunal constitucional y el estatuto básico del empleado público solo da al estado competencias sobre las retribuciones básicas de los funcionarios por supuesto con una tarea

al estado por tanto el incremento congelación o decremento debe ser siempre

por tanto los incrementos decrementos o congelación deben ser realizados de la manera que estimen conveniente de acuerdo con su autonomía financiera las comunidades autónomas por lo tanto el artículo dos del real decreto ley no puede ser considerado

excede de las fronteras en las que ha de moverse en núcleo básico

siempre y el artículo dos de este real decreto convierte de manera forzada la paga extra en retribución básica y esta nunca lo es

el artículo ciento cuarenta y nueve punto uno punto dieciocho y el artículo ciento cincuenta y seis establece la intervención estatal posible y legitima

siempre que se ciña a limitaciones rigurosas que impidan el vaciamiento de la competencia exclusiva y luego hay otro aspecto también que es la tesis que siempre hemos defendido desde el gobierno vasco que es la de la concurrencia normativa que también forma parte de la jurisprudencia del constitucional

no se desplaza la norma autonómica esta sigue siendo vigente y solo

y por lo tanto en euskadi solo cabe aplicar la ley de presupuestos vigente del año dos mil doce por lo tanto los finiquitos

están debidamente abonados y es por eso por lo que no veíamos y no entendíamos por qué este punto debía ser incluido en el orden del día de la mesa general de los trabajadores del gobierno vasco porque si está debidamente abonado y el derecho asiste a los trabajadores si lo incluimos en el orden del día estamos implícitamente reconociendo que está sometido a negociación

otra cosa es que todos cualquier merma de derechos cualquier cuestión relacionada con los trabajadores deba ser y acordada en la medida de lo posible en la mesa general que es el órgano para ello y por eso en la enmienda transaccional que hemos alcanzado mi grupo y nacionalistas vascos

a través bien de la mesa general o bien de cualquiera de las mesas sectoriales y a negociar todas las cuestiones relacionadas con ellos y que también supongan posible merma de derechos consolidados y también hay otra cuestión importante

importante que para cualquier decisión relacionada con la paga a los interinos el sector público siempre a lo que se diga en la sentencia del tribunal constitucional porque puede darse el caso señoras y señores que el tribunal constitucional levante o no la suspensión dentro de cinco meses y puede darse el caso que el gobierno vasco en caso de que la suspensión

decida que tiene derecho a reclamar la paga extra a los interinos y no es esa la cuestión porque si han atendido a las tesis

está bien abonada la paga extra de interinos y por lo tanto hay que estar en todo caso a cuando se dicte la sentencia por parte del alto tribunal y luego otra cuestión que reiteradamente mi grupo ha defendido es que en previsión

en este año dos mil trece de la paga del dos mil doce debería de estar

suficiente para poder abonar la paga extra que en su momento en diciembre del dos mil trece no pudo ser abonada por la suspensión del tribunal constitucional

la posición del grupo socialista y eso es lo que se recoge en la enmienda transaccional que hemos alcanzado con el grupo nacionalistas vascos de lo cual me alegro

mis dudas porque a las empresas del sector público se les ha pasado una carta

y a los interventores diciéndoles que no provean en los presupuestos de sus empresas de sus sociedades públicas ninguna cantidad referida a la paga extra del dos mil doce en sus presupuestos para el año dos mil trece espero que esta enmienda acordada hoy aquí sirva para solucionar ese tema estaremos muy atentos a la letra de los presupuestos que se presenten

hoy me quedo con la satisfacción del acuerdo alcanzado y no puedo no tengo no puedo evitar citar hoy aquí que sí sería

reivindicasen que en la negociación de los sindicatos y la diputación estuviese presente en el orden del día este punto el punto de la paga extra de los interinos porque a diferencia de los trabajadores del gobierno

pero las normas de la diputación tienen rango de reglamento de decreto y por lo tanto tiene preeminencia el real decreto ley y eso lo sabían en la diputación de bizkaia porque evidentemente los servicios jurídicos de la diputación de bizkaia

y a lo que hemos asistido es a una trampa y a un engaño por parte de la diputación del diputado general y de sus

para engañar a la ciudadanía vizcaína y a los trabajadores públicos de la diputación de bizkaia porque sabían que no les iban a abonar la paga

a los interinos que trabajan para la diputación les abonaron la paga extra

el gobierno vasco en todo momento cumplió con la legalidad vigente lo correcto lo que tenía que hacer porque nos asiste la razón nada más y muchas gracias

aurkako ordainketak izan zirelakoan en relación con todo este problema

hará todo lo que esté en manos de este gobierno para que los trabajadores de la administración pública vasca no se vean obligados a devolver la parte proporcional de la paga extra que

en ese sentido ha añadido también ser consciente de este problema y ha asegurado que se está trabajando desde el primer día para que no se tenga que proceder a exigir la devolución de lo cobrado asimismo

también ha asumido reiteradamente su compromiso para que en el caso de que

el constitucional falle finalmente contra la obligatoriedad del cumplimiento de la medida impuesta por el gobierno de españa el ejecutivo vasco abonará la extra de navidad a todos los trabajadores afectados beraz

demandamos al gobierno vasco presidido por el lehendakari urkullu que en su actuación tenga presente el principio de seguridad jurídica

del ejecutivo en todo momento precisamente para no ocasionar mayores perjuicios a los afectados entendemos que la mejor opción antes de adoptar cualquier decisión sobre la exigencia de los trabajadores de la devolución de la paga extra es esperar

asimismo creemos necesario que el gobierno vasco cuente en sus presupuestos para el año dos mil trece

desde aquí instamos al gobierno vasco a no cesar en la defensa de autogobierno uste dugu

sí gracias presidenta con su permiso desde el escaño de manera muy breve únicamente para adelantar que pediríamos la votación por puntos

a votar a favor de los puntos número dos y tres efectivamente parece razonable que se pida al gobierno vasco que mantenga una relación permanente con los representantes de los trabajadores y obviamente también parece razonable

si ustedes permiten la votación por puntos estaríamos dispuestos a votar a favor de esos dos puntos

gracias señora presidenta muy buenas tardes señorías yo creo que una de las cosas que más nos molesta en general a todos es que

algo que se nos había advertido que pudiera ocurrir termina ocurriendo y además tenemos que escuchar

de lo que estamos debatiendo aquí de la iniciativa que estamos debatiendo es verdad y no lo voy a obviar el origen está en la decisión del gobierno de españa que se vio en la obligación de tomar medidas urgentes que tuvieran efectos inmediatos entre los que se encontraba precisamente la supresión de la paga extra de navidad decisión que como tuve ocasión de manifestar en el pleno de diciembre al que ya se ha hecho referencia en esta tribuna es una decisión

que no quisiéramos haber tenido que tomar pero que era la más ponderada desde un punto de vista social a partir de ahí una decisión que debe ser

como también dije en su día a partir de ese día tuvimos un baile entre diferentes grupos entre diferentes partidos y tuvimos que asistir a lo que

un baile entre todos en el que cada uno de los partidos políticos que tenían que tomar decisiones en aquel momento ese baile en el que cada uno intentaba esconder la cabeza debajo del ala

y en este contexto desde el partido popular exigimos en aquel momento que se diera seguridad jurídica eso es lo que pedimos una y otra vez

repercutían directamente en personas y hoy nos encontramos aquí con que con

estamos y se ha generado un perjuicio a unas personas nosotros en su día pedimos que se fuera responsable y que se fuera leal con una decisión que entendíamos era complicada

con el agravante de que no estamos o por lo menos no creo que se tenga la misma situación que altos cargos que han podido cobrar una paga extra de navidad y que la tienen que devolver estamos en una situación como ya se ha dicho aquí de personas que concluyen sus trabajos con la administración

un finiquito de manera improcedente yo señorías les tengo que decir que venía con mucho interés para ver cuáles eran los argumentos que se daban por parte de los grupos parlamentarios para pedir lo que se está pidiendo

en esta enmienda de transacción porque realmente lo que están pidiendo es que se mantenga una situación de ilegalidad

es decir la señora mendia dice que están perfectamente pagados esos finiquitos

por qué el resto de funcionarios no han tenido que esperar hasta la sentencia del tribunal constitucional y hubieran podido percibir

es que yo sinceramente les he escuchado atentamente he apuntado lo que ustedes nos han dicho

el recurso que presentó el gobierno vasco del señor

que está muy convencida de que tomaron la decisión correcta y que además el tribunal constitucional les va a dar la razón

claro es que realmente no puedo entender cómo desde un parlamento se le insta al gobierno vasco a mantener una situación irregular con un doble perjuicio para estas personas porque no solo han recibido un finiquito que no les corresponde sino que además

van a hacer la declaración de la renta y si después se demuestra por la sentencia que no han cobrado debidamente es un doble perjuicio

yo realmente intento escuchar sus argumentos y no lo puedo comprender

al gobierno que mantenga una situación irregular y luego ya entramos en otros aspectos

que no puedo dejar de entrar señora mendia por que cuándo hicieron dejación de sus obligaciones como gobierno

cuando rebajaron un cinco por ciento el sueldo y entonces no dijeron absolutamente nada

porque de repente se dieron cuenta en la última etapa del gobierno

es que es muy poco creíble su postura pero la de los dos porque mire la suya entiendo que ahora es la demagógia y lo entiendo desde la oposición bueno cada uno sabe

pero que el grupo que sustenta al gobierno le pida al gobierno

irregular no lo puedo comprender no lo puedo comprender sobre todo generando una inseguridad a esas personas

por lo tanto yo voy a ver si

de más peso que los que han dado hasta ahora más allá de la demagogia porque sino lo que nos quedará es preguntarle al gobierno vasco

al posible mandato que salga hoy de aquí muchísimas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzunen txanda eh bildu taldearen

señora mendia por qué hay que negociar en la mesa general de la función pública este punto pues porque es el foro donde hay que negociar las condiciones laborales

sector público y respetarlo y no como hizo usted el tres de febrero donde acordó con la mayoría sindical un acuerdo y lo incumplió el once de junio

piensa que es un tema jurídico que nosotros pensamos que es un tema político de voluntad política pero aún pensando que fuese un problema de legalidad

la sala de lo social de la audiencia nacional ya está dudando de la legalidad de este decreto

sobre si este tema de no abonar la paga extraordinaria es legal besterik ez

señora quiroga argumentos de más peso difícilmente salvo que usted no haga caso omiso de la jurisprudencia al tribunal constitucional le parezca que es una jurisdicción que no es necesaria en este país en fin

determinadas sentencias extractadas jurisprudencia sentada reiterada del tribunal constitucional por lo tanto mayor seguridad jurídica que esa le puedo asegurar que es difícil de encontrar

no le quepa duda que sobre este tema el gobierno vasco ha actuado fundado en derecho y fundado en informes jurídicos sensatos

las personas que trabajan en el ámbito del régimen jurídico y de la asesoría jurídica en el gobierno son personas muy válidas que no hacen argumentos en el aire ni piruetas en el aire es decir cuando te establecen algo en un papel es

perjuicios a personas no se ha causado ninguno por parte del gobierno vasco porque hay que diferenciar dos aspectos porque yo no sé si es que usted no se lee los periódicos supongo que sí pero se ha olvidado de un matiz importante algo que ocurrió que fue a instancias del gobierno de españa que fue acudir al tribunal constitucional para pedir la suspensión

por el cual se pagaba la paga extra de diciembre a los funcionarios de carrera por lo tanto separemos los dos ámbitos el ámbito de los interinos que como le digo

general a negociar que es si está bien pagado está bien pagado lo que yo quiero garantizar con mi enmienda

si la suspensión de la paga extra de los funcionarios de carrera no se levanta en los cinco meses que queda para que el tribunal constitucional pronuncie no venga al gobierno vasco y le reclame a los algo que no se tiene que reclamar porque el tribunal constitucional no ha entrado al fondo del asunto al fondo del asunto que le he narrado al principio de mi intervención que era

del ámbito competencial autonómico ese es el fondo del asunto y en el fondo del asunto no le quepa a usted duda señora quiroga

de que me tendrá que decir usted que el gobierno vasco tenía razón por lo tanto eso es lo que ha ocurrido y

el gobierno del partido popular que con el acelerón que metió a sus servicios jurídicos incluso al consejo de estado

en el tiempo en el que la paga estaba en tránsito y se suspendió y ahora lo que está en cuestión

es si se levanta esa suspensión o no por el tribunal constitucional pero sin resolver el fondo del asunto no se olvide una cosa es la mera formalidad del pago o no pago

porque sabe usted por la retahíla de recursos que está teniendo el gobierno del partido popular están ustedes invadiendo las competencias autonómicas no solo en esta cuestión sino en muchas otras porque aquí también tendremos ocasión seguramente de hablar de las treinta y siete horas y media

por lo tanto estese tranquila porque aún en el hipotético caso de que hubiera llegado tarde el gobierno de españa a la suspensión del acto administrativo y no nosotros hubiéramos pagado la paga extra el tribunal constitucional no hubiera exigido la devolución de la paga y ni siquiera lo exigirá cuando dicte sentencia y si no pues pregúntelo y luego lo clásico ya lo esperaba que lo sacase

y se lo he explicado en mi primera intervención por qué porque aquel estaba bien hecho y no invadía

al salario base y los trienios y no se metía en cómo pagan las comunidades autónomas

que es donde se han metido ustedes que es otro charco diferente fruto de las prisas y de la unilateralidad desde la que ustedes legislan desde la moncloa y nosotros lo hicimos diferente además porque nos tomamos la libertad de no obedecer el real decreto de zapatero al pie de la letra para no perjudicar a los trabajadores vascos y solo les bajamos en escala salario más bajo hasta el salario más alto el dos coma cinco por ciento no el cinco por ciento

fue con una reducción del salario diferido de la aportación de los trabajadores a itzarri por lo tanto señora quiroga

a ningún trabajador estaba bien hecho se ceñía a las competencias del estado salario base

eskerrik asko señora quiroga ahorrese esa solidaridad y esa responsabilidad mal entendida

la señora mendia hacia los servicios jurídicos del gobierno vasco yo creo que estamos aquí tratando

se les ha incluido la cantidad proporcional de la paga extra de navidad que no se les tenía que haber incluido porque es que yo no sé si le he entendido bien pero usted ha llegado a decir que no existen tampoco entonces ya no sé que estamos haciendo aquí

es que usted misma aquí ha dicho que no existen si no lo sabe usted entonces qué hacemos aquí

que efectivamente no se devuelva nada a esas personas

existen o no existen qué estamos haciendo aquí debatiendo sobre esto mire yo creo que es una irresponsabilidad lo que están haciendo y sobre todo porque usted

trasladar a estas personas lo fía todo a la sentencia del tribunal constitucional

sensato y responsable en un estado de derecho porque por supuesto que la voluntad política es la que tiene que tomar las decisiones pero eso se tiene

en un parlamento y en una ley y la ley se tiene que cumplir y lo que tenemos que hacer es cumplir esa ley

no dejar de cumplirla que es lo que ustedes están planteando aquí y lo que le están diciendo al gobierno vasco que

en tanto en cuanto no tengamos una sentencia pero es que además ya el siguiente punto

este gobierno vasco ha cogido un mantra que es el de

menos mil doscientos millónes de euros lo tenemos todos muy interiorizado

presupuesto y ahora aquí se nos está proponiendo que una determinada cantidad la dejemos ahí aparcada para por si acaso

yo realmente les pediría responsabilidad con este tema todos sabemos que es una situación complicada

y aunque sea solo porque acaban de salir del gobierno vasco que saben cómo está la situación

han estado en el gobierno y cuando ustedes están sosteniendo al gobierno vasco no lo podemos entender

por hacer demagogia y como he dicho en mi primera intervención

es preguntarle como vamos hacer al gobierno vasco si

va a dar cumplimiento porque esa también será una respuesta muy interesante para escuchar muchísimas gracias

señorías muy brevemente también para decir que finalmente hemos firmado esa enmienda de transacción

abordar un debate serio y efectivamente la necesidad es hacerlo tratando de que ese nuevo plan para la promoción y el uso del euskera sea un plan que busque el acuerdo que no sea un plan para la imposición sino que sea un plan que busque el consenso desde el partido popular desde el grupo popular pensamos que es necesario en esta nueva etapa

y posibilitar un plan que de verdad refleje la realidad la pluralidad de la sociedad vasca y las diferentes realidades de nuestra comunidad solo cabe un acuerdo en nuestra opinión si se garantiza la libertad de opción de los ciudadanos

de opción en todos los ámbitos de la vida en el ámbito laboral en el ámbito social en el ámbito escolar y en el ámbito familiar

opción de los ciudadanos solo además si se respeta

solo si se respeta de una manera efectiva más allá de lo que se ponga en un papel porque muchas veces

en el papel lo aguantan casi todo pero luego lo que tenemos que garantizar es que esos derechos que reclamamos se puedan garantizar de una manera efectiva y creemos que es preciso de verdad tratar de garantizar de esa manera efectiva que se atienda de verdad y que se garantice

las diferentes realidades socio lingüísticas de nuestra comunidad

se hizo tabla rasa nosotros no tenemos miedo al debate pero desde luego no compartimos muchas de las cuestiones que asumió el gobierno socialista como propias al aprobar ese plan nosotros presentaremos propuestas de resolución creo que al final hoy lo único que se trataba era

y agilizar el trámite parlamentario para que podamos en comisión debatir sobre ese plan para que podamos realizar aportaciones y para que veamos efectivamente si hay voluntad por parte de los grupos mayoritarios y por parte sobre todo el gobierno si hay voluntad

un gran pacto un gran acuerdo nosotros presentaremos

que hay muchas cosas que compartimos pero también hay muchas otras que nos separan de las conclusiones del plan elaborado por el consejo asesor del euskera tendremos oportunidad de defender esa posición

como lo hemos hecho siempre en materia lingüística por último vamos a seguir manteniendo que el euskera el castellano las lenguas nuestras lenguas

y que los sujetos del derecho somos los ciudadanos vascos las lenguas no son sujeto de derechos los derechos los tenemos las personas y yo creo que cualquier plan de promoción y de uso del euskera tiene que respetar sobre todo y garantizar
ese derecho y la libertad de las personas nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna mistoa upyd taldearen

muchas gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios seré breve en la exposición de esta iniciativa que pide un trabajo al tribunal vasco de cuentas en relación con una cuestión que para nosotros consideramos importante

euskadi se constituyó el siete de febrero dos mil tres como una gran empresa automovilística que todos conocimos en aquel momento por su

inicial como supuesta protagonista de grandes metas y de posibles grandes consecuciones en el ámbito de la formula uno

automovilística y con posterioridad

todo fue una quiebra un fracaso sin precedentes en la industria vasca un fracaso sin precedentes que estuvo auspiciado que estuvo secundado lamentablemente por las administraciones

foral la vasca la municipal la central

el pasado año pero no pudo sustanciarse por la disolución de esta cámara y por conocer a fondo todas las responsabilidades

fallida al margen de las responsabilidades puramente empresariales pues es por donde nosotros establecimos esta línea de trabajo en relación con esta cuestión

profundamente la legislatura pasada esta cámara

también en comisiones pero nosotros entendemos que el trabajo en relación con esta cuestión aún está pendiente en buena parte epsilon euskadi ha sido una empresa que ha recibido numerosos apoyos económicos de diferentes administraciones públicas esta empresa

el siete de julio de dos mil once tras agotar los tres meses de situación preconcursal argumentando que se hallaba en una situación de insolvencia y que no podía cumplir sus obligaciones de pago

para toda su plantilla se inició la fase de liquidación decretada por el juzgado

afrontando unas deudas muy importantes el gobierno vasco también

que el concurso de epsilon fuera declarado culpable así como la inhabilitación profesional durante cinco años del gestor de la compañía que recibió ayudas tanto del ejecutivo de vitoria como de las otras instituciones de euskadi como la diputación foral de álava el ayuntamiento de vitoria en total muchos millónes de dinero público comprometidos en un proyecto que intentaba situar a euskadi en la vanguardia

muy mal parece que de una manera como un gran fracaso

los titulares de los periódicos y de la prensa que ha seguido de cerca

el propio consejero anterior del gobierno vasco el señor bernabe unda pues ya efectivamente fue conocedor y trabajó desde luego

ha tenido base económica un informe jurídico avala que las ayudas podrían considerarse de estado por la unión europea el parque de miñano decidió su apoyo a epsilon

los informes jurídicos sobre las ayudas a epsilon confirman las irregularidades el gobierno ratifica sus sospechas de posibles irregularidades en epsilón bien una comparecencia también clarificadora del consejero unda en esta cámara pues ya dijo que esta operación la operación de epsilon no era una operación de futuro

emprendida por el parque buscaba tapar un quebranto económico de una incorrecta

una operación que nace de una esperanza fallida decía unda también decía que el parque decide en tiempos de crisis y sin encomendarse a nadie

también decía el consejero que centró una parte de su intervención en lo que

que son al fin y al cabo los que maneja el parque el dinero de todos los ciudadanos

y como han salido muchas cifras sobre ayuda pública le gustaría dejar claro que según sus estimaciones y los informes de las entidades financieras las ayudas públicas han sido del orden

de las diferentes administraciones bueno ahí están los datos nosotros podemos seguir encargando que se investiguen estas cuestiones que forman parte

en relación con una actuación clara que financiada y subvencionada por las administraciones o sea que nosotros tenemos el deber de estar vigilantes en estas cuestiones no solamente nosotros también las juntas generales de álava en pleno el día cinco de noviembre de

también estuvieron preocupados por el asunto y hacían un llamamiento al análisis a la investigación de las irregularidades vuelvo a decir hace cuatro meses

una enmienda transaccional en relación con una moción donde daba trabajo desde luego a las juntas a la propia diputación foral

algunas cuestiones puntuales y bueno pues nosotros queremos seguir ampliando esa información

dice que la iniciativa en el ejercicio de la función fiscalizadora corresponderá al parlamento vasco a este pleno y al propio tribunal vasco de cuentas públicas el primer caso se realizará a través del pleno del parlamento vasco el segundo a través del programa anual

obligará efectivamente al tribunal a realizar este trabajo y por eso nosotros sometemos a la consideración de esta cámara la siguiente proposición no de ley que es que el parlamento vasco requiere al tribunal vasco de cuentas públicas herri kontuen

que realice un informe de fiscalización de las ayudas subvenciones prestamos y avales concedidas por las administraciones

el año pasado el año que acabamos de cerrar dos mil tres es el año en el que se constituyó bueno en ese análisis entendemos que no puede haber más que claridad

que se hayan movido en la insolvencia o en la irregularidad pública pues no vuelvan a producirse de nuevo espero su apoyo nada más muchas gracias

que puede contar con nuestro valioso escaño para la aprobación de esta iniciativa gracias eskerrik asko maneiro jauna

no podemos mas que posicionarnos de acuerdo por supuesto que estamos de acuerdo con que se fiscalicen de una vez las ayudas subvenciones

pero a esta y a todas las demás por un lado están claras las consecuencias económicas directas que este proyecto ha dejado en las arcas públicas vascas y no solo eso lo que se ha demostrado con este fracaso y utilizando un eslogan propio del sector del automóvil

la voluntad y las políticas mediáticas fracasan ya que de la buena voluntad es evidente que no se puede vivir este es un ejemplo más de las empresas que han desaparecido

armoniosa con la administración pública y sobre todo con el dinero público del que eran dependientes

para conseguir beneficios que luego no han sido redistribuidos socialmente

el marco del hacer política económica a golpe de titular qué pasa que para que epsilon tuviese sentido había que avalar un prestamo pues se avalaba

pues se hacen que hay que proponer traer la fórmula uno a araba más concretamente hacer un circuito en araka para que la empresa tenga mayor sentido pues por qué no y no olvidemos que son este tipo de empresas las que realmente

pues bien sencillo porque ni los autónomos ni las pymes plantean ideas tan descabelladas y que les obliguen a contar con millónes y millónes de euros en inversiones sin planes reales de viabilidad empresaria ni del proyecto pero no es lo mismo invertir en formula uno que en economía productiva está claro

este no es el debate de hoy pero sí que centra los modelos de emprendizaje que se subvencionan desde las administraciones públicas basado en lo individual y no en el bien económico y social común

y siempre en busca de la repercusión no económica sino mediática de los proyectos especulativos

ondorioak parece que hoy es en el proyecto hiriko donde vuelve a repetirse la historia y muy tristemente parece que como siempre será la ciudadanía

y de políticos ciegos por los focos y sin miedo a las repercusiones

pero no tiene consecuencia alguna cuando escucho la palabra fiscalización que aparece en la ponencia

responsabilidad aquí es hora de buscar ya de una vez culpables

se pidió la inhabilitación del gerente de epsilon por su nefasta gerencia parece apropiado empezar a buscar las responsabilidades internas dentro de esta casa y en las que soportaron conjuntamente este proyecto fraudulento

más intereses a la ciudadanía vasca pero parece que ya se ha pedido su inhabilitación como gerente y se ha exigido varias veces además auditorias de su modelo de gestión y como ya he dicho y repito se pide su inhabilitación profesional pero dónde están los demás implicados en este turbio asunto qué ha sido del director de los parques tecnológicos

los prestamos con las antiguas y tristemente extintas cajas públicas vascas vital y kutxa

está a su vez imputado por otra parte en el caso de miguel caso muy conocido en araba pues parece que en este caso tristemente una vez más

la metáfora de la puerta giratoria y esta vuelve a funcionar

por lo que parece con dinero público y es que en cuestión de días fue contrastado pasando de lo público

sin problemas ni incompatibilidades no ya por su actuación en este caso

pues bien y ahora desde la preocupación cómo es posible que una persona que sale cuestionada por su praxis en su anterior puesto de responsabilidad como director de los parques tecnológicos del país vasco en el caso epsilon en otro caso entre directamente en cuestión casi de días como gerente de una empresa privada y encima a tratar con la administración pública y conseguir convenios

es importante eliminar o por lo menos regular mejor cuáles son las incompatibilidades por un lado en el que incurre una persona tras pasar por un cargo público

de los implicados es necesario hacer un seguimiento de dónde y qué relaciones contractuales existen hoy en día entre estas personas y las administraciones públicas

dureza que con el gerente de epsilon y en esto desde euskal herria bildu queremos

para que nos haga llegar toda la información relativa a los convenios de colaboración existentes con esa empresa porque nos llena de desconsuelo pensar que desde dos mil diez una persona imputada en caso de corrupción

egoerak ezabatu behar dira administrazioarekin harremanak izaterako orduan algún día deberemos aclarar todas las responsabilidades emanadas del caso epsilon

alentaron y dieron vida a este proyecto desde los cargos de responsabilidad públicos lo debemos hacer por dignidad democrática

y de respeto a la ciudadanía que será en última instancia quien pague finalmente las consecuencias de lo que ha sido un fracaso social y económico para esta sociedad eskerrik asko

arratsalde on guztioi sí me gustaría empezar pidiéndole al señor lópez de munain

le agradecería que leyera lo que día a día entra en este parlamento este martes pasó por la mesa del parlamento vasco el último informe del tribunal vasco de cuentas en donde se analiza en profundidad la operación del parque tecnológico por lo tanto es ilógico que usted

del tribunal vasco de cuentas nire lehenengo interbentzio

es en momentos de dificultad cuando se miden la fuerza de los planteamientos políticos relacionados con la apuesta por disponer

y puntero y hoy vamos a hablar de un caso que debiendo ser atendido como merece por su gravedad por la gravedad de los hechos que todos conocemos lo tenemos que situar en el balance global de apuestas de nuestras instituciones por el progreso

y por la generación de actividad económica constante sin duda la misión que se encuentra en el adn de nuestras instituciones es lo que nos ha hecho y nos volverá a hacer fuertes

ha sido uno de los proyectos con mas proyección que se han pretendido desarrollar en la comunidad autónoma

era un proyecto según los expertos que tenía potencialidad para generar conocimiento y desarrollos tecnológicos de alto nivel que pudiesen ser trasladados a otros sectores de actividad

y desarrollos tecnológicos de alto nivel en el sector de la automoción que pudieran ser atendidos en otros sectores de actividad el proyecto desde los primeros momentos sedujo a los tecnólogos de las instituciones vascas así también como a los del ministerio de educación y ciencia que se convirtieron

en concreto la infraestructura del túnel del viento ya había sido detectada como un nicho potencial de la oferta tecnológica necesaria en el país vasco ese túnel del viento que varios de los aquí presentes en este hemiciclo

oportunidad de conocer físicamente junto al proyecto global para entiendo seguir apostando por la iniciativa como así se ha estado haciendo hasta ahora una apuesta decía enmarcada en otras muchas apuestas industriales que nos caracterizan como país hay otros gobiernos en cambio que deciden colocar sus aspiraciones de progreso económico en uno o dos sectores principalmente y cuando uno de esos dos sectores cae por una crisis

financiera pues el país se paraliza también no es nuestro caso en euskadi

en euskadi siempre hemos apoyado los nuevos proyectos industriales que cubrieran los vacíos sectoriales e incluso que permitieran complementar

en euskadi siempre hemos estado abiertos a nuevos proyectos y yo desde mi condición de parlamentaria de margen izquierda veo hoy como imprescindibles para hacer una nueva reconversión

proiektu baten aurrean gaudenean el proyecto de epsilon tuvo los parabienes de instituciones identidades financieras en varios ejercicios

de las administraciones públicas obviamente con esos mimbres si una administración como la del ministerio recorta hasta en un ochenta por ciento

empiezan como es lógico a aparecer los problemas pero ese recorte influyó solo a epsilon en el año dos mil ocho parece ser que no porque multitud de proyectos de base tecnológica cuyas ayudas se aprobaron y se pagaron en dos mil ocho cayeron

empezó a caer epsilon en ese momento ese hecho fue el que marcó el porvenir del proyecto y que posteriormente no se supo parar a tiempo y digo que

a sabiendas de que empezaba a tener problemas hablo de los años dos mil nueve dos mil diez y dos mil once en el año dos mil nueve se aportó

cuatrocientos veinticuatro euros a través de los programas gaitek y net en el año dos mil diez se aportaron a epsilon

a través también de los programas gaitek y net y uno millón y medio como subvención del ministerio en el año dos mil once el ministerio también a través de

al proyecto epsilon y en el ministerio también en el año dos mil once le da quince millónes al proyecto hiriko

el veinte por ciento pero la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo y que nos trae el partido popular a este pleno hace referencia a requerir al tribunal vasco de cuentas para que haga una fiscalización por si las ayudas fueron legales

señor barrio todas y cada una de las ayudas que epsilon ha recibido han sido fiscalizadas por cada órgano competente en ello lo sabe perfectamente el tribunal vasco de cuentas ha fiscalizado las ayudas económicas que le corresponden y el gobierno vasco a través de su oficina de control económico y de su propia intervención

se ponían en marcha a través de programas de convocatorias por lo tanto todas las ayudas

en ello se podría decir que la operación fue fallida por diferentes circunstancias por un lado la carga de financiación pública la crisis financiera la crisis en la automoción sobre todo la imposibilidad de entrar en el mercado de soporte a la formula uno etcétera pero no señor barrio por la ilegalidad en la concesión de las ayudas o por la ilegalidad

de álava existen informes de fiscalización tanto de la concesión de las ayudas

del parque tecnológico por lo tanto ilegalidad alguna no la hay pero es más esa ilegalidad está corroborada porque existen informes es decir no es necesario ningún informe más es posible que podamos debatir sobre el histórico del caso epsilon cosa que ya se ha hecho en más de una ocasión en esta

barrio que la pasada legislatura llevó usted el caso pero sobre todo podría ser interesante debatir ese histórico para que podamos tomar las medidas correctoras correspondientes

de ayudas de otras instituciones o para que ningún gobierno vasco siendo consciente de la posición financiera delicada de epsilon comunicada ya en el año dos mil nueve en el siguiente ejercicio dos mil diez y dos mil once hubiera seguido aportando

en cualquier caso insistimos desde nuestro grupo que proyectos industriales de base tecnológica apoyados por nuestras instituciones están dando magníficos resultados y que reconociendo la operación fallida de epsilon

deben seguir siendo la guía de actuación para los próximos años posiblemente con una combinación más acertada de la financiación

por lo tanto por todo lo explicado y porque esta misma semana hemos recibido el informe del tribunal vasco de cuentas en el que se explica el caso epsilon la operación del parque tecnológico en profundidad y porque ya existen de años anteriores los informes correspondientes del tribunal vasco de cuentas públicas

dando explicaciones sobre la concesión de las ayudas no podemos apoyar esta iniciativa por lo que en principio y si aún habiendo iniciado este debate señor barrio siguen manteniendo esta iniciativa nosotros

sí gracias señora presidenta desde el escaño con su permiso y brevemente

el informe reciente del tribunal de cuentas que llegó

puntual de una de las expresiones que forma todo este conglomerado de ayudas y de actuaciones público privadas y desde luego ahí está va a servir pero esto formará parte de lo que nosotros

un análisis que todavía no ha sido exhaustivo en relación con las ayudas recibidas

por eso yo pido esa información todos además

lo exitoso de las actuaciones en relación con el desarrollo de nuestra industria como no

pero también tenemos que analizar lo que son los fracasos las irregularidades los defectos y las vulneraciones de procedimientos las ilegalidades eso tenemos que analizarlo también y por eso nosotros con esta voluntad

integral exhaustivo en relación con la legalidad de esas ayudas desde la fecha de constitución de esta empresa hasta el dos mil doce yo creo que eso abunda

para luego efectivamente hacer lo que usted a dicho para seguir debatiendo porque sí que seguiremos debatiendo yo creo que

de lo que podría ser además una comisión de investigación no lo es de momento de momento nos movemos en el análisis y en el estudio pero sí que podría ser

a lo largo de la legislatura cómo va la cuestión ha habido actuaciones

algunas se han hecho mención aquí yo no quería poner de manifiesto porque quiero saber antes

el asunto es que se puede saber más por qué ha salido mal dónde está la irregularidad dónde está la responsabilidad conocer

de euros es decir que estamos hablando de cifras ya importantes y además conocer cuestiones para que no se vuelvan vuelvo a decir a vulnerar procedimientos

y eso es lo que va a hacer este parlamento muchas gracias eskerrik asko barrio jauna jarraian

iba a intervenir en la explicación de voto pero parece que no está muy claro si

era para decir que los socialistas íbamos a votar a favor de la propuesta que hace el

realmente sencillo lo que se está pidiendo es que se fiscalice

es cierto que hay reiteración sobre algunas de estas cosas que se han venido preguntando es cierto también que ha habido una fiscalización reciente y que también hay

que además hace poco se ha resuelto para que el tribunal vasco de cuentas haga su plan de trabajo anual en fin yo creo que estaba todo en marcha y que se podía haber hecho sin necesidad de

entendíamos que no se trataba de hacer ningún histórico

a quienes han estado gestionando todo esto sino que se trataba exclusivamente de decir sí

pudiera fiscalizar y como este es un acto tan sencillo nos parecía que casi con el sí era suficiente eskerrik asko prieto jauna

bai a la señora corrales evidentemente que era un proyecto interesante en un proyecto donde el capital privado

y está subvencionada en unos cincuenta millónes de euros tres de capital público

no es más que interesante es que yo lo que no sé es cómo siendo tan prioritario para esta comunidad autónoma

directamente porque es que ya solo faltaba que encima metiesemos mas dinero

o ha hablado como si siguiese abierta esta empresa esta empresa ha sido cerrada está

está siendo imputado ha sido intentado imputar por este mismo gobierno y tendremos que saber ahora de qué estamos hablando y luego me gustaría preguntar por otro lado

existe alguna voluntad por su gobierno

de tomar las mismas medidas con el anterior director de los parques tecnológicos de euskadi sí o no es sencillo

existe la voluntad de llevar esto adelante y

los convenios de colaboración y financiación que tiene el gobierno vasco

con la empresa que ahora mismo gerencia sí o no eskerrik asko lópez de munain jauna eta amaitzeko

andrea señor representante de

vayamos al grano y no desviemos el tema si usted quiere hacer esa pregunta cuando empecemos los plenos de control

al gobierno y el gobierno le responderá pero vayamos al grano y no mezclemos temas porque usted mismo ha dicho está imputado

investigando y la justicia dirá lo que tiene que decir el partido popular nos dice que el trabajo aún está pendiente que el análisis no ha sido exhaustivo qué entiende el señor barrio por exhaustivo

voluntad de saber lo que ha pasado se puede saber más señor barrio usted de todas formas habla de oído porque si pregunta

la valoración la tasación de los terrenos y del propio edificio de epsilon está siendo ha sido más alta que lo que es el prestamo que ha

para sí mismo eso es cierto y puede haber incluso una diferencia positiva de seis millónes de euros por lo tanto esa diferencia esa pérdida que ha citado usted de cincuenta millónes de euros

porque ese dato no es correcto y

venir y retirar una iniciativa a sabiendas de que todo lo que pide está hecho lo único que el tribunal vasco de cuentas no ha fiscalizado son las ayudas

esas son las que no ha fiscalizado y no porque no las haya fiscalizado teniéndolas que fiscalizar

al tribunal corresponde fiscalizarlas a la oficina de control económico y a intervención del gobierno y así fue

cuando tuvo que ser fiscalizada y controladas dichas ayudas por lo tanto señor barrio no quiera pedir usted algo que ya está hecho

una iniciativa a sabiendas de que lo que pide está hecho ya porque rectificar es de sabios y para terminar creo que es importante recalcar la necesidad de seguir apostando por las actividades industriales que generen

actividad de especialización actividad de conocimiento y por supuesto que entre todos mejoremos los controles de gestión de esas inversiones públicas que nos permiten

que es fundamental para no colisionar o no depender de

prioridad o tienen modelos productivos diferentes por lo tanto sigamos apostando por las actividades industriales que generen un valor añadido y que generen más actividad económica ese es el momento en el que estamos ahora mismo por el apoyo